presidenta señora consejera le pregunto por el fraude cometido por bildu en san sebastián en lo que se refiere a la elección de la directora de san sebastián dos mil dieciséis

fraude al fraude o si va a mirar para otro lado en virtud de algún tipo de pacto a varias bandas no sabemos cuántas para tapar el asunto que sepa en todo caso la consejera que nosotros queremos llegar hasta el final

y a san sebastián y a euskadi no es la opacidad ni que se tapen corruptelas habidas sino que haya transparencia cuanta más mejor

upyd pidió tres comparecencias que se sustanciaron en la comisión de cultura hace unas cuantas semanas

quien contestó muy amablemente y generosidad a las preguntas de todos los grupos de la directora del proyecto de capitalidad europea la propia itziar

consejera de educación para que en fin todos ellos pudieran dar

y en su caso intentar aclarar las sospechas de fraude en el proceso de nombramiento de la directora del proyecto de capitalidad europea de la cultura de san sebastián dos mil dieciséis y escuchadas sus versiones las dudas en relación al proceso que derivó en la elección de nogueras se acrecentaron

esas dudas creo que varios grupos lo observamos con nitidez y así lo expresamos en la propia comisión y en nuestro caso como iré explicando además de fraude observamos la posible

secreto para tapar el escándalo los silenciosos responsables de eh bildu y del partido nacionalista vasco en esa comisión lo cierto es que fueron muy reveladores fueron silencios estruendosos le adelanto nuestra versión de los hechos que puede dividirse o resumirse en dos afirmaciones en nuestra opinión nos encontramos ante un fraude monumental y en nuestra opinión también existe un pacto

para taparlo repasemos los hechos el pasado día veinte de junio de dos mil trece el proyecto donostiarra de capitalidad cultural europea perdió a su principal referente técnico

que ocupaba desde noviembre de dos mil nueve el cinco de julio distintos medios de comunicación informaban de que todo está preparado para que el cargo de nueva directora general del proyecto lo asuma itziar nogueras

tiene adjudicada desde al menos quince días la nueva dirección general del proyecto aunque trate de disfrazar lo que es una designación a dedo con un proceso de selección externo literalmente se decía en alguna información concreta que bildu amarró este nombramiento de confianza antes incluso de que la hasta ahora directora general eva salaberria presentara su renuncia

dos mil dieciséis fue el pasado día veinte de junio la misma tarde del abandono de salaberria el alcalde de bildu de san sebastián trasladó a los miembros de la fundación su deseo de abrir un proceso independiente para seleccionar

y que pudiera cerrarse cuanto antes para afrontar la recta final hacia

presentó las bases del concurso al que nadie se opuso todo parecía correcto

el veintitrés de junio y al que se presentaron dieciocho personas el puesto de mayor responsabilidad de gestión ya estaba bildu encargaba el supuesto proceso de selección a lks pero un medio en cuestión presenta como prueba del supuesto fraude un correo electrónico

el veinte de junio a sus compañeras de la fundación elhuyar horas antes de la renuncia

para que asuma la dirección de donostia dos mil dieciséis un tren que no podía dejar pasar ese mismo día el día en que se publica esa información el ministerio de cultura pedía aclarar el amaño se decía de bildu en san sebastián

del patronato de la fundación san sebastián dos mil dieciséis con el fin de saber qué ha ocurrido con el concurso público para el relevo de la directora del proyecto de la capitalidad europea los grupos municipales del partido socialista de euskadi y del partido popular con buen criterio también pedían explicaciones

la inmediata suspensión del proceso de elección del director del proyecto si queda la más mínima duda de la transparencia en la sustitución de salaberria

remitida un día antes por el comité ejecutivo de la fundación san sebastián dos mil dieciséis de la que también forma parte el departamento y la institución foral cultura difundía su propio comunicado al día siguiente de que la fundación asegurase que el proceso avanza según el calendario marcado con total transparencia y objetividad

candidatos para revelar a salaberria y mantuvo contactos con varias personas cultura insistía en exigir al patronato de la fundación reunirse esclarecer los hechos días después tras la reunión extraordinaria del patronato de la fundación del día once de julio tanto el ministerio como el gobierno vasco descartaban un amaño en la elección de la nueva dirección el encuentro concluyó tras dos horas y media de explicaciones por parte de la empresa encargada del proceso selección el comunicado remitido por la fundación decía lo siguiente la exposición y las aclaraciones ofrecidas por la empresa de selección acerca del desarrollo del concurso han sido satisfactorias para todos los miembros del patronato de la fundación y se han ofrecido todas las garantías de que dicho proceso es imparcial y objetivo

en la comisión de cultura de este parlamento concluimos todo lo contrario y no por las actuaciones de dicha empresa sino por todo lo que esta empresa nos contó y nos dijo por todo lo que nos contó el responsable de lks pero también por todo lo que nos contaron ustedes usted misma y la nueva directora de san sebastián dos mil dieciséis en todo caso los argumento de la empresa de selección que no transcendieron fueron suficientes para que el ministerio del gobierno conformes el veintitrés de julio se reunió el patronato de la fundación para escuchar la propuesta presentada por la empresa de selección la compañía trasladó a las

para desempeñar el cargo y el patronato así lo acepto sin embargo al día siguiente el partido socialista de euskadi afirmaba que el proceso se ha cerrado en falso el partido popular lo calificaba de rocambolesco y el partido nacionalista vasco consideraba necesarias aclaraciones

no es lo más adecuado pues bien desde entonces lo que tenemos es y es entonces cuando nosotros pedimos las comparecencias más adelante se conocía el informe elaborado por el jurado internacional

elaborado antes del nombramiento de la nueva directora ese informe recuerda que el éxito del dos mil dieciséis está vinculado a su independencia política y mostraba serios motivos de preocupación el documento mostraba por distintas razones

ayuntamiento diputación departamento de cultura ministerio de cultura ya le digo que por diferentes razones este

ese informe señala que la nueva dirección general de donostia dos mil dieciséis debería recaer en alguien con una aprobada experiencia

internacionales de similares dimensiones y el jurado señalaba que espera que la selección se efectué mediante un proceso de selección transparente y abierto vayamos a los requisitos establecidos en la convocatoria pública convocada después de que la persona posteriormente elegida ya se le hubiera ofrecido el cargo

universitaria experiencia amplio conocimiento de la cultura vasca y euskera

ese trabajo el gara berria noticias de gipuzkoa y diario vasco divulgación por tanto claramente limitada ningún medio nacional y mucho menos ningún medio extranjero resumen de los hechos que a la directora actual el alcalde de bildu un puesto antes de que se convoque el indispensable concurso público y dos que finalmente esa persona es elegida directora

que no pasa nunca que a la persona elegida se le ofrezca antes el cargo que la difusión de la convocatoria pública fue ciertamente insuficiente

y que era extraño que no se exigiera inglés y una experiencia más concreta para poder acceder al cargo estos son los hechos es decir no son opiniones o rumores estas son las cosas que han ocurrido que creo que usted también conoce perfectamente y está de acuerdo con la exposición ya digo que son hechos no son opiniones

en la comisión de cultura en nuestra opinión este proceso se ha cerrado en falso no se han aclarado en absoluto las sospechas de fraude al revés

no podemos mirar para otro lado ya digo por el bien de san sebastián por el bien de euskadi y por el bien del propio proyecto en fin

tenemos la comunicación a nogueras el correo electrónico el alcance de la convocatoria pública

el desenlace que efectivamente esta persona es finalmente la elegida y la actitud también de los distintos partidos políticos y de las propias instituciones que pasan

a de repente callar pensamos que ha habido un fraude ha habido un proceso de selección localista teledirigido y fraudulento y que finaliza con la persona

y creemos también que ha habido un pacto de silencio pedimos por lo tanto a la consejera
que nos aclare todos estos hechos y qué va a hacer el gobierno para aclarar esta cuestión gracias eskerrik asko maneiro jauna

presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi señor maneiro hace menos de un mes

comparecí a petición suya en la comisión de cultura con la intención de aclarar cualquier duda que pudiera existir en relación al proceso de nombramiento de la directora del proyecto de capitalidad

donostia san sebastián dos mil dieciséis ante dicha comisión comparecieron también como usted bien ha citado la directora del proyecto

considero que en aquella ocasión siendo el foro más adecuado para ello se facilitó toda la información relativa al proceso y se respondió a cuantas cuestiones se plantearon

las explicaciones dadas hasta el momento con el único fin de esclarecer las posibles dudas que pudieran existir al respecto

azaldu zuenez como es de suponer esta decisión influye y acelera el planteamiento y reflexión que se estaba realizando en torno al posible cambio a realizar en la dirección de la oficina de la capitalidad cultural donostia dos mil dieciséis une horretan hainbat aukera aztertzen hasi zen

de la selección el pasado veinte de noviembre tuvimos la ocasión de escuchar al representante de dicha empresa ratificar dicha decisión ante la comisión de cultura

afirmó claramente que la candidata cumple con los requisitos en todos sus ámbitos quedando por así decir el segundo candidato a una distancia apreciable en cuanto a la evaluación tal y como se reflejaba además en las puntuaciones obtenidas y presentadas en el informe y que no tenía ninguna duda de que la candidata seleccionada era la que con diferencia mejor cumplía los requisitos

así pues y a modo de resumen tan solo una frase el gobierno vasco como miembro del patronato ha ejercido

su labor de apoyo vigilancia y colaboración necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto para ello se ha valido en todo momento del necesario asesoramiento jurídico velando por la total objetividad legalidad y transparencia del proceso

ante esta cámara desde el convencimiento de que han sido suficientemente esclarecedoras eskerrik asko uriarte andrea

gracias presidenta usted no ha despejado ninguna duda al revés acrecienta nuevamente los rumores de fraude

diferentes comparecientes no ya tanto sus versiones sino los hechos porque ya digo nadie duda de cuáles han sido los hechos los hechos son objetivos lo que es ciertamente de extrañar es que el gobierno

mirar para otro lado cuando los hechos evidencian lo que evidencia es decir de decir que

el proceso se adecue a la legalidad vigente y sea limpio a repentinamente mirar para otro lado y mantenerse en el silencio por lo tanto usted y ustedes no aclararon nada

todo lo contrario no dieron ninguna explicación no despejaron ninguna duda los medios de comunicación al día siguiente lo vieron

dos mil dieciséis la oposición insiste en el parlamento vasco en su sospecha sobre el proceso de selección de la nueva directora de donostia dos mil dieciséis todos nos fuimos de aquella comisión mucho más preocupados de como entramos esta es la realidad esta es la realidad

los hechos como fueron y de los hechos concluimos evidentemente que ha habido un fraude monumental y no solamente que ha habido un fraude sino que hay un pacto a varias bandas que habría que concretar para que no se sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido y ese fraude quede como está quede tapado creo que fue bastante

que prefirió no hacer ninguna pregunta y el silencio también de la representante de eh bildu que tampoco preguntó absolutamente nada a los comparecientes una cosa ciertamente sospechosa por lo tanto los hechos son los hechos y tengo que insistir al gobierno y preguntar otra vez si ustedes

para tratar de despejar las incógnitas que detrás de este asunto se ciernen por que son evidentes estas sospechas en fin

en nuestra opinión ya digo es un fraude monumental el alcalde de san sebastían de bildu

el cargo antes de convocar la convocatoria pública a usted esto no le parece extraño el proceso de selección fue limitado y localista únicamente se publicó en berria gara

ningún medio de ámbito nacional es decir en lugar de ampliar el alcance de la oferta se limita en lugar de ampliar el alcance de la oferta para que se puedan presentar

para que se pueda elegir al mejor entre todos ellos lo que se hace es limitar la selección y el alcance de esa convocatoria y esto a usted no le parece extraño respecto a los requisitos claramente insuficientes licenciatura experiencia europa pedía

dimensiones se obvia esta recomendación y esta exigencia de europa únicamente se pide experiencia y se pide evidentemente amplio conocimiento de la cultura vasca y euskera sin embargo no se pide inglés no se pide experiencia a la hora de dirigir programas internacionales de similares dimensiones y tampoco se pide el conocimiento del inglés ambos asuntos parecen evidentes que son necesarios

de estas características a usted esto tampoco le parece extraño al representante de lks y al resto de grupos de la oposición sí nos parece ciertamente extraño y nos parece ciertamente extraño que los diferentes partidos políticos y diferentes instituciones hayan pasado de la critica contundente a cómo se hizo

sin que pasará absolutamente nada entre una cosa y otra no hubo ningún tipo de aclaración no se aclaró nada

deciden callar ante esto que nosotros consideramos un fraude y las instituciones

muy sospechoso por lo tanto pedimos al gobierno que no mire para otro lado y que observe qué es lo que efectivamente ha ocurrido a nosotros nos da la sensación por lo tanto es más que una sensación que aquí ha habido un fraude monumental y que hay un pacto de silencio a varias bandas para que no se pueda despejar lo que aquí ha ocurrido

que investigue el asunto y que no mire para otro lado eskerrik asko maneiro jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa

señor maneiro puedo estar de acuerdo con usted en que las cosas se hayan podido hacer de otra manera

pero considero totalmente injusto que hable usted de falta de transparencia y de fraude y que base su intervención en valoraciones opiniones

el gobierno vasco ha llevado a cabo en todo momento las labores de apoyo vigilancia y colaboración que le corresponden como miembro del patronato para el adecuado desarrollo del proyecto ese es nuestro compromiso esa es nuestra responsabilidad en aras a conseguir el éxito que merece este proyecto

que por desgracia ha resultado afectada negativamente por las circunstancias pero en ningún caso dichas circunstancias han tenido repercusión alguna en el trabajo realizado ni en su decisión final

así lo constató el responsable de la empresa contratado para tal fin y le diré más señor maneiro nadie

no ha habido nunca ningún intento de direccionar a la empresa y no es justo que usted trate de acusarnos de tales circunstancias precisamente en busca de la mejor de las organizaciones se ha llevado a cabo el proceso de selección que hoy nos ocupa

se ha valido en todo momento como ya he citado del necesario asesoramiento jurídico y la total objetividad legalidad y transparencia en el proceso

alcancen el mayor de los éxitos el proceso fue rápido sí

la anterior directora ya había hecho público su cese en el cargo por tanto era inminente la necesidad de buscar una persona que la pudiera sustituir y esto no coincide en tiempos con

es decir el veinte de junio se acordó en el patronato por unanimidad

así como para dotar a la fundación de los correspondientes servicios de dirección artística facultando al alcalde

para determinar la forma en que deben llevarse a cabo dichos procedimientos y desarrollándolos en todas sus fases hasta la suscripción de los correspondientes contratos laborales o prestación de servicios

tal y como ya he mencionado con anterioridad en el patronato se realiza una reflexión en relación a la dirección de la capitalidad

directora de la oficina de la capitalidad informara de su decisión de no seguir en el cargo en dicha reflexión

por su parte dicha dirección general así mismo debiera contar con el apoyo de los servicios de dirección cultural muy potentes el patronato

iniciar los correspondientes procedimientos para proveer la plaza de director general

así como para dotar a la fundación de los correspondientes servicios de dirección artística en ese mismo patronato con el acuerdo del ayuntamiento la diputación el ministerio y el gobierno

y para ello se tomó como base los perfiles y requisitos que se habían utilizado para los entonces miembros del equipo de dirección

en el aspecto que cita del hecho de que se emitan dos notas no quiere decir que estas notas sean contrarias sino todo lo contrario son complementarias

se emitió una nota por parte de la capitalidad mediante la cual se quería trasladar y garantizar la absoluta transparencia y de manera complementaria y para reforzar aún más la garantía de transparencia el gobierno vasco emitió una nueva nota insisto complementaria en la que además de insistir en el correcto funcionamiento del proceso

y llegado el caso suspenderlo ante la más mínima sospecha maneiro

en ningún caso implica que el proceso no haya sido limpio debe quedar claro que nadie insisto nadie

el proceso de selección y eso es importante una vez iniciado el proceso de selección el proceso ha sido impecable y la empresa contratada para tal fin es decir lks

nuevamente repetirle se acuerdan en el patronato inicia los procedimientos y se le facilita al alcalde

determinar la forma de llevar a cabo el concurso en todo caso el perfil definido

se acuerda en el propio patronato y es el mismo

el mismo representante de lks afirmó que el hecho de que el euskera fuera un requisito incuestionable podía lleva a la lógica de publicar en los periódicos regionales

buenos días a todos señora consejera como usted sabe inspectores de trabajo dependientes del ministerio de empleo y seguridad social han estado realizando en las últimas semanas en los últimos meses múltiples visitas a centros educativos de nuestra comunidad autónoma estas visitas se han concentrado sobre todo en álava y en concreto en algunos centros escolares de vitoria

están dados de alta en la seguridad social y en consecuencia proceder a regularizar toda la actividad extraescolar un espacio consagrado al trabajo voluntario de padres madres y monitores de hecho algún centro ya ha sido sancionado como es uno céntrico en la ciudad de vitoria

han decidido suspenderlos por un tiempo y hasta que se resuelva este problema y mientras tanto miles de escolares ven amenazadas sus actividades extraescolares deportivas en el ámbito de los servicios que se prestan en los centros educativos existen diferentes situaciones hay monitores

y ejercen funciones de programación coordinación y supervisión de los programas de deporte escolar en el centro en otros muchos casos los monitores perciben una modesta compensación económica

quedan relegadas a la difusa figura del voluntariado y carecen de toda seguridad como de protección laboral la ley diecisiete barra mil novecientos noventa y ocho de veinticinco de junio del voluntariado del país vasco

recibir digo textualmente recibir una compensación económica por los gastos realizados en el desempeño de su actividad siempre que así se haya establecido en las condiciones pactadas entre el voluntariado

sin embargo los monitores como voluntarios deportivos solo podrán intervenir con organizaciones privadas sin animo de lucro es decir clubes deportivos agrupaciones deportivas asociaciones de régimen general que estén legalmente constituidas dotadas de personalidad jurídica propia y debidamente inscritas en los correspondientes registros habida cuenta de que esa situación de impasse se está condicionando y limitando la actividad de todos los agentes relacionados con el ámbito deportivo escolar

para conocer qué tiene previsto hacer este gobierno con el colectivo que forman los monitores y las monitoras en este ámbito existen colectivos que hablan de un posible intrusismo pero está claro que si no se requiere legalmente de ninguna titulación

que no hemos de poner en juego la seguridad de menores ni su desarrollo integral durante la infancia y la juventud la educación física como todos sabemos en la escuela ofrece una excelente oportunidad de aprender y practicar una serie de destrezas que contribuyen potencialmente a mejorar la condición física y la salud a lo largo de toda la vida no obstante la educación física no se limita al entrenamiento de destrezas

y conceptos tales como reglas del juego el juego limpio el respecto conciencia táctica y corporal así como la conciencia social asociada a la interacción personal y el trabajo en equipo

es de vital importa que todos los responsables de los programas deportivos

sean conscientes de las repercusiones que las experiencias deportivas puedan ocasionar en la formación integral de nuestros jóvenes el deporte per se no es educativo

entrenador o monitor aunque sin duda son también fundamentalmente las aportaciones de padres federaciones

para evitar problemas y garantizar un aprendizaje deportivo de calidad es indispensable que la figura del monitor se someta a una regulación formativa y profesional de su actividad tenemos referentes legislativos cercanos en tiempo y espacio me refiero a la ley tres barra dos mil ocho de veintitrés de abril del ejercicio de las profesiones del deporte en cataluña

es pionera y puede tomarse como base de desarrollo de cualquier legislación posterior

que el actual gobierno en la presentación del calendario legislativo de veinticuatro de octubre del presente año anunció que elaboraría un anteproyecto de ley sobre el ejercicio de profesiones del deporte en el país vasco y que

los socialistas consideramos que la tramitación de esta anunciada ley sería un marco adecuado para discutir y encajar eso que llamamos monitores o voluntariado deportivo pero suponemos que esta ley como lo indica su definición regulará solo el ejercicio profesional

que es quien realiza las actividades técnico deportivas de manera totalmente altruista y desinteresada sin remuneración y con la única compensación de los gastos derivados de su actividad

del sector y que exige la participación de entes públicos y privados y asociativos del deporte que generan bajo su responsabilidad ofertas laborales dirigidas a los profesionales del deporte

de conocer las certificaciones necesarias para desarrollar su actividad dentro del marco legal de su profesión todos los gestores deportivos deberán adaptarse al nuevo mapa de profesiones que afectará de manera directa a la plantilla pero también a las posibles consecuencias ante un incumplimiento el tema fue objeto de debate el pasado cuatro de noviembre de dos mil trece en la comisión de cultura

la iniciativa presentada por eh bildu relativa a la normalización de la formación reglada del deporte escolar decayó por falta de acuerdo

para hacer frente al problema y por el que presentamos esta interpelación

un informe de situación leo el acuerdo adoptado por los dos grupos mencionados que

analice el cumplimiento y desarrollo en el ámbito de la formación del deporte escolar ni tampoco como dice el segundo punto de la enmienda

y en la formación del deporte escolar elabore un plan de acciones para la mejora de la formación de las personas que actúan en el deporte escolar

acorde con las necesidades del deporte escolar en la comunidad autónoma vasca las necesidades están claras así lo reconocía con datos cuantitativos el portavoz del grupo nacionalista vasco

es decir un sesenta y siete coma ocho por ciento y todos los años se incorporan en la actividad de enseñanza deportiva unas mil setecientos personas sin ningún tipo de preparación esta realidad entendemos

y además con la máxima celeridad antes desde luego del primer semestre de dos mil quince el problema ha surgido cuando ha surgido y la respuesta debiera ser rápida por parte de este gobierno como decía esperamos que antes del primer semestre del dos mil quince en el que se remita la ley al parlamento vasco para su tramitación porque la comunidad escolar así lo demanda

y formativa y de la que dependen nuestros menores y su desarrollo educativo porque desde luego nadie acudiríamos a un centro médico a ser atendidos por alguien que no tuviera la suficiente preparación

y no fuera lo suficiente profesional para poder atender

por tanto no creo que a nadie nos guste o nos apetezca o entendamos que es lo más correcto que nuestros hijos desarrollen las actividades extraescolares deportivas por personas que quizás en la mayoría de los casos o en algunos

señora rojo me pregunta usted a cerca de los propósitos que tiene el departamento de educación política lingüística y cultura

para comenzar le diré que a pesar de no tener competencia directa en esta materia es un tema que al departamento le preocupa

como usted bien sabe las actividades extraescolares son organizadas por las asociaciones de padres y madres y se llevan a cabo fuera del tiempo lectivo además

llevadas a cabo en los centros escolares no tienen relación directa con el currículum a pesar de ello les otorgamos un gran valor en la medida en que resultan necesarias para completar la educación mejoran las competencias interpersonales y producen un gran beneficio en la preparación del alumnado para la vida adulta lo cierto

y una filosofía educativa y deportiva que se remonta a décadas atrás la inspección estatal de la inspección de trabajo y seguridad social y más concretamente su dirección general

en diversos centros escolares ante la medida adoptada en el ámbito estatal

a instancias de la federación de asociaciones de padres y madres el departamento de educación política lingüística y cultura contactó inmediatamente con el departamento de empleo y políticas sociales para tratar de recabar información y buscar alguna solución eskolaz kanpoko jarduerak egiten diren orduetan gauzatzen ari dira

eta denbora eskaintzen duten pertsona horien kontra estamos hablando de padres madres antiguos alumnos y alumnas personas que llevan a cabo una encomiable

sin ningún ánimo lucrativo más que alguna pequeña retribución simbólica como usted ha citado

debe quedar claro que estas actividades suponen una de las mejores vías de participación y colaboración que las familias tienen en el objetivo educativo de la comunidad escolar además esta fórmula de participación de las personas voluntarias en las actividades extraescolares proporciona y posibilita la transmisión de valores positivos

valores que debemos fomentar y ensalzar si queremos ser consecuentes con nuestro planteamiento global de escuela inclusiva y de educación para la convivencia

están apoyadas y protegidas seguros regulación etcétera

el seguro contratado por el departamento cubre el resto de las actividades extraescolares cuando están incluidas en los programas de actividades extraescolares y complementarias aprobadas por los centros

conviene aclarar en primer lugar que la competencia en el desarrollo normativo de la política deportiva dirigida a la promoción del deporte escolar corresponde a las diputaciones forales en base al artículo cinco de la ley catorce barra mil novecientos noventa y ocho del deporte del país vasco zure galderan esan duzu

la obligación de llevar a cabo la correspondiente contratación del personal para desarrollar las actividades extraescolares en el ámbito deportivo sin distinciones se traduciría en un considerable descenso

además se estaría dificultando una de las vías de colaboración y participación de las familias en la actividad del centro educativo en consecuencia

está llevando a cabo en estrecha colaboración con la viceconsejería de trabajo y empleo del gobierno vasco cuantas gestiones están en su mano para encontrar una solución a la problemática suscitada

gracias otra vez presidenta bien señora consejera escuchada su intervención lo que queda claro es

entendemos y compartimos la importancia del papel que desempeñan las personas que se dedican

hasta ahí todo de acuerdo pero lo que está claro es que existe un problema hoy los centros tiene un problema los padres afectados tiene un problema

escolares que están viendo cómo esas actividades extraescolares están desapareciendo por lo tanto entiendo que no huyendo del debate de las competencias estamos aquí para plantear soluciones soluciones una es acelerar la ley que la ley llegue antes

ya que es un compromiso planteado por el gobierno vasco entendemos que como todo la política también es una cuestión de prioridades y si surge el problema creo que debiéramos

kirolene depende del gobierno vasco es un centro dependiente del gobierno vasco y en ese centro sí podrían impartirse cursos para que

y así evitar el problema que están sufriendo hoy lo que está claro es que es evidente que hay un déficit claro que afecta a la prestación de servicios deportivos y eso no lo discute ni su gobierno ni lo discute el grupo socialista el colectivo de monitores

y lo demandan porque lo que no quieren es ni dejar de impartir esos cursos de extraescolares ni acabar perjudicando al colectivo escolar que al final son las primeras víctimas de este problema pero esa normalización laboral ha de venir acompañada y necesariamente de una regulación de su profesión

carecen de una categorización de su profesión y tampoco tienen unas funciones vinculadas claras esta solución

porque definiría en primer lugar aquellas categorías profesionales entre las cuales se incluiría la de esos monitores y en segundo lugar esta ley establecería las titulaciones necesarias

a cada una de las profesiones ello obligaría a los profesionales que vayan a trabajar sin titulación oficial en el mundo del deporte a seguir unos pasos de certificación de su profesión o en el caso contrario se contaran fuera del marco legal para realizar la prescripción y realización de actividad física a terceros con esta ley la ley que reclamamos que llegue antes se resolvería las situaciones que afectan a la calidad y seguridad de los servicios deportivos se evitaría el intrusismo de profesionales ajenos al sector de hecho el intrusismo formalmente definido en el código penal consiste en ejercer actos propios de una profesión sin tener la titulación requerida

en medicina acorde con las tareas que va a desempeñar pues lo mismo ocurre con los monitores usted ha concluido su intervención hablando de un trabajo conjunto que están trabajando desde el departamento que usted lidera y el departamento de trabajo que están realizando gestiones para intentar

y si las gestiones que están realizando ustedes van a ser las que pongan en el camino de la solución a este problema porque podemos hacer todo tipo de gestiones podemos quedarnos en el debate de si somos competentes o no somos competentes en que vamos a traer una ley que parece que va a llegar de aquí a año y medio

lo que acaba pasando con estas cosas pero entre tanto el problema está sin solucionar las multas económicas están llegando a los centros y al final acaban siendo los padres los que acaban pagando porque

y kilorene que es quién podría dotar a los monitores de este curso

por lo tanto entendemos que con la solución en la mano no sabemos por qué el gobierno vasco no se pone a solucionarlo por tanto lo único que le quisiera preguntar para concluir

y si existe la solución que todos entendemos cuál es la solución por qué este gobierno no lo pone ya sobre la mesa nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea erantzuteko

señora rojo el departamento de educación política lingüística y cultura está preocupado por la decisión de la inspección estatal de la inspección de trabajo y de seguridad social de ejercer una labor de control con respecto a la labor que desarrollan los monitores de actividades deportivas en los centros ikastetxe desberdinetan aurrera

juega un papel trascendental en el ámbito de las actividades extraescolares y no solamente estamos hablando de monitores y de titulaciones de deporte estamos hablando también de voluntariado

establece que se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas siempre que se realicen en las siguientes condiciones

voluntaria y libremente a través de organizaciones sin ánimo de lucro y con arreglo a programas o proyecto concretos sin retribución económica

todo indica que la actividad de la que estamos hablando puede en una buena parte de los casos

por ello el modelo de documento del acuerdo establecido en el decreto

es una de las vías que estamos analizando es una de las vías no la única en cualquier caso el departamento se encuentra en la actualidad en conversaciones con las federaciones de ampas y con el departamento de empleo y políticas sociales del gobierno vasco

se ha contactado incluso con la dirección general de la inspección de trabajo y seguridad social aukera guztiak aztertzen ari gara

señora presidenta señora consejera para ser un gobierno

volvemos nuevamente a preguntar por un asunto que tenía tintes de pasado pero que una vez más el nacionalismo lo centra en el presente y lamentablemente lo pone de actualidad

el rey como máxima autoridad del estado felicita las fiestas

sus propias reflexiones respecto a la situación presente y futura de nuestro país

y dirigido a la sociedad en su conjunto que el monarca realiza a lo largo de cada ejercicio durante la anterior legislatura y bajo mandato no nacionalista

tras décadas de omisión y de reiteradas negativas a emitirlo por parte de los nacionalistas

aires de cambios y sobre todo un signo inequívoco de normalidad política e institucional en el seno del último consejo de administración del ente público vasco su directora la señora iturbe anunció sin dar grandes explicaciones que este año no se iba a emitir

decisión que lógicamente este grupo parlamentario no comparte y no la compartimos porque la normalidad democrática debe ser el signo y la bandera de todo gobierno que dice respetar la pluralidad existente en este país y si hay un territorio donde existe una gran diversidad de pensamiento y de ideologías

y por tanto los responsables públicos a la hora de adoptar determinadas decisiones deben tener en cuenta esos criterios de pluralidad y no dejarse llevar exclusivamente por las demandas

de estas mayores explicaciones y esperando recibirlas de usted le preguntamos señora consejera cuáles son los motivos los verdaderos motivos por los cuales
han decidido no emitir este año el mensaje de navidad del rey en la televisión pública vasca eskerrik asko

que lo leo literalmente recientemente en el seno del consejo de administración de e i te be la directora del ente público

desde el partido popular además de no compartir dicha decisión desconocemos los motivos que han impulsado al gobierno vasco a la adopción de la misma lehenik eta behin

quisiera una vez más y de una manera clara afirmar que el gobierno vasco no es quien decide ni los programas

hau da cuáles son los motivos que han llevado a la dirección de e i te be a suspender y no emitir el mensaje del rey honen inguruan hainbat gogoeta egin nahi dut en el periodo comprendido entre mil novecientos ochenta y tres y dos mil doce de treinta años y por tanto a su vez a lo largo de treinta navidades y de posibilidades de emitir el mensaje de navidad del rey e i te be

y no se ha retransmitido en veintiséis berriro esango dut hogeita hamar aukeretatik

zein erabaki hartzeko orduan en lo que se refiere a la toma de decisión de dos mil trece

de suspensión ya que en esa afirmación se podría sobrentender que en algún momento ha habido o hubo alguna aprobación vinculante para la actual dirección circunstancia que obviamente no se da

y el percibido de sus treinta años de historia eskerrik asko

menos convincentes de las que me lo esperaba la realidad es que detrás de esta decisión y de esta posición política no se esconde sino razones puramente políticas y quiero decirle señora consejera que el rey es la máxima autoridad del estado pero es que el lehendakari

la presidenta de este parlamento es estado la propia de e i te be como ente público

también es estado y por tanto le diré que el rey

merece un tratamiento y un respeto institucional por parte de todos

es el estado consideramos que detrás de esta decisión al margen de audiencias y de las nulas justificaciones que ustedes han pretendido dar

ustedes con este gesto lo que persiguen es negar la legitimidad que tiene el rey como máxima autoridad institucional también aquí en euskadi con su negativa a emitir el mensaje del rey buscan ofrecer un gesto de rebeldía

interno pero su planteamiento va más allá y lo que realmente pretenden a través

es hacer una peineta política a eso que ustedes llaman el estado español pero creo que yerra el tiro porque lo que realmente manifiesta su actitud es un gesto

en este país a ustedes que tanto le gusta hablar de futuro y de convivencia con este tipo de decisiones

si realmente apuestan por un futuro en paz y en convivencia es hora de que avancen en posiciones y no permanezcan encorsetados en posiciones políticas impensables en países
modernos a esos que ustedes le gusta apelar como dinamarca noruega u holanda eskerrik asko llanos anderea eskerrik asko erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

no consta que exista ninguna solicitud institucional o profesional avalada mayoritariamente que requiera considerar la decisión

e i te be está en disposición de escuchar cuantas aportaciones se realicen en ese sentido y está dispuesto a valorar las mismas si concitan un amplio consenso social
y tienen el respaldo de la sociedad vasca eskerrik asko uriarte

señora presidenta bien en octubre pasado se cumplían dos años desde que eta decretó el cese definitivo de su actividad criminal la noticia fue acogida por todo el arco político vasco con alegría y con esperanza pero también en lo que respecta a este grupo político

vividas anteriormente aunque han permanecido comportamientos violentos han sido dos años sin atentados y sin muertes del que todos los vascos hemos podido disfrutar es evidente que todos los representantes públicos y el conjunto de la ciudadanía mantenemos

la sociedad en su conjunto en el ejercicio de nuestras responsabilidades políticas nos exige que hagamos lo posible para apuntalar definitivamente esta situación

durante años no vuelvan a repetirse lo hemos dicho hoy mismo en esta cámara y lo quiero reiterar hoy aquí el futuro debemos construirlo

éticos y sobre un forjado y unas estructuras que superen con nota los test de resistencia ante cualquier movimiento sísmico que pudiera producirse

de basar en un compromiso inequívoco con la memoria con la dignidad y con la justicia el futuro de la sociedad vasca no puede erigirse ni en la desmemoria

de amnesia colectiva o con un presente desvirtuado el futuro

por reconocer el pasado por realizar un ejercicio de autocrítica y por efectuar una reflexión profunda sobre la falta de principios y de valores éticos en los que se han sustentado determinados comportamientos

pero a su vez apostamos por un futuro como decía cargado de dignidad

como una sociedad madura reflexiva y democrática y para ello debemos escribir la narrativa de lo ocurrido durante las últimas décadas sin olvidar

sin dejar que el epílogo lo escriban quienes tanto daño han causado en este país por lo tanto un relato fiel a la verdad

y la justicia pero lamentablemente señora consejera la realidad es bien distinta y por parte de determinado espectro ideológico existen fuertes reticencias a abandonar las posiciones las actitudes y los comportamientos del pasado y no únicamente por su nula voluntad a realizar una

sino porque a tenor de lo que estamos viendo en las últimas semanas algunos pretenden volver a una metodología que parecía olvidada para otros algunos

los sabotajes los actos de bienvenida y homenaje a quienes no merecen honor alguno

y querían dar un prisma escandaloso de normalidad algunos

hemos asistido a un repunte claro de los actos de kale borroka

a personas condenadas por múltiples asesinatos de recibimientos y de homenajes señora consejera actos de kale borroka y de ataques a las sedes de partidos políticos que suponen un ataque a la línea de flotación de la democracia y suponen un intento a la desesperada de atentar contra la libertad del conjunto de la ciudadanía

y los poderes públicos están en la obligación de preservarlo con todos con todos los medios a su alcance la democracia no puede permanecer impasible totalitarismo de quienes no persiguen sino amedrentar coaccionar

tenemos que expresar alto y claro que hemos cumplido hace mucho tiempo la mayoría de edad y que no necesitamos tutelajes de nadie y mucho menos de quienes no sienten ningún respeto

señora consejera no podemos permitirnos ni puede usted permitir actos de recibimiento a modo de homenaje como si de honorables servidores a la comunidad se tratara a criminales condenados por múltiples asesinatos que habrán salido de la cárcel pero siguen siendo criminales y terroristas y señora consejera la permisividad

o en el peor de los casos su comprensión y definición que hoy no se ha negado aquí como

nos degradan como sociedad y ante las actuaciones que estamos viendo en las últimas semanas caben dos actitudes una consiste en ponerse

en asumir que todo ello forma parte del paisaje habitual de euskadi

como en muchos tiempos y todavía hoy por algunos pretenden que los tomemos y la segunda consiste en revelarnos en mantener una posición

prevenir combatir y perseguir a quienes mantienen actitudes y comportamientos rechazables desde un plano ético y lamento expresar señora consejera que no he visto esa actitud de insumisión en usted ni en su departamento ante los homenajes

de su partido en lo referente a la kale borroka nos vemos en la obligación de exigirles algo más que las simples condenas mucho más

deben ustedes prevenirlas perseguirlas y ponerlas a disposición judicial a sus autores y nos vemos en la obligación no por dar gusto a nadie

de actitudes sujetas a responsabilidad penal prevengan y actúen para evitar que se produzcan suponen una afrenta moral para las víctimas y por extensión para el conjunto de la sociedad señora consejera

petrificada en su atalaya institucional sabedora como es de que cada excarcelación de un miembro de eta viene acompañada y vendrá acompañada

de esos recibimientos y de esos homenajes

no esperamos nada absolutamente nada de ese espectro ideológico pero sí debemos exigirles a ustedes como partido democrático y a usted como consejera de seguridad que prestigie las instituciones y que honre a las víctimas impidiendo los actos mencionados y también

como valor supremo incardinado en nuestra sociedad por todo ello señora consejera quiero preguntarle qué medidas piensa para prevenir combatir y perseguir a quienes vulneran nuestras libertades qué medios de la policía vasca ha puesto a disposición para que como le diga se puedan prevenir combatir y perseguir estos actos de kale borroka y qué medidas

piensa adoptar para dignificarnos como sociedad e impedir actos de homenaje a miembros de eta a la espera de su respuesta nada más y muchas gracias

usted dice algunos parece que no se atreven a despegarse del pasado bueno pues me quedo con esa frase señora

la persecución y la prevención de violencia callejera o kale borroka señora llanos es una preocupación y objetivo permanente

cuestionar esto hablar de tolerancia hablar de inacción

de prevaricación usted cree que los funcionarios de la ertzaintza que los ertzainas no hacen su trabajo

como corresponde usted cree que no cumplen y hacen cumplir con la ley eso es lo que usted ha venido a cuestionar aquí usted cree que esa es la manera de prestigiar las instituciones le diría más

contra este gobierno usted y su partido en cualquier caso le he dicho la kale borroka es un objetivo permanente de la ertzaintza la violencia en general

actuación y lo va a seguir siendo siempre mientras persista la mínima expresión no le quepa a usted ninguna duda este es nuestro deber y nuestro compromiso nuestro compromiso con la sociedad y así lo avala la eficacia policial

se ha enfrentado durante todos estos años a estas situaciones de violencia

y con sufrimiento en carne propia a lo que se ha enfrentado durante todos estos años sigue y seguirá enfrentándose mientras exista la más mínima expresión

también está ahí en ese compromiso con la sociedad en ese deseo

democrática que nadie recurra a la violencia y rompa a su antojo las reglas de juego democráticas las reglas democráticas de convivencia

mire vamos a contextualizar este dos mil trece no ha sido en lo que va de año

situaciones que no son muy lejanas en el tiempo pero tampoco se puede negar

las evidencias es este tipo de expresiones violentas persisten y a la vista están los hechos

casos y persisten con ciertos modos operandi que

bueno no siempre facilitan su catalogación policial pero que también nos recuerdan épocas pasadas

de actos de violencia callejera se trata de ataques sabotajes e incidentes que van asociados a protestas

muchos de estos actos la mayoría han ido contra entidades bancarias fundamentalmente han sido ataques con pinturas siliconas e incluso en algún caso lanzamiento de piedras o de líquido inflamabel pero la mayoría de los casos

explícito que permitiera definir la identidad política o ideológica de los autores o asignar una autoría organizada estructurada y colectivamente identificable este tipo de actos violentos contra entidades bancarias se han producido a lo largo de todo el año pero especialmente durante los meses de abril y mayo

reivindicaciones sociales reivindicaciones estudiantiles concentraciones de protesta convocatorias de huelga la violencia que se ha detectado y analizado policialmente en estas circunstancias poco difiere por desgracia de la que también se ha producido en otros lugares de la geografía española a lo largo de este año y es cierto

registrados por la ertzaintza en lo que va de año catorce de ellas presentan características

o indicios que se pueden corresponder con lo que

en estos casos en estos catorce casos la ertzaintza ha abierto diligencias ha elaborado los correspondientes atestados y ha comunicado inmediatamente a la audiencia nacional

actuar y en relación a su preocupación a la preocupación que ha motivado esta pregunta señora llanos en este último mes se han quemado dos banderas españolas y una europea ha habido algunas barricadas y cortes de carretera ataques a entidades bancarias se han producido dos fuertes de catenaria se han quemado contenedores han aparecido

y en una ocasión el pasado veintinueve de noviembre en barakaldo en la sede del partido popular

recibió el impacto de dos cócteles molotov dicho esto es evidente

he descrito que ha tenido un carácter más próximo a lo que hemos venido catalogando como kale borroka en concreto las acciones a las que me refiero han estado asociadas con pancartas pintadas panfletos protestas

si bien ninguna de ellas insisto ninguna de ellas ha llevado la firma de asociación u organización alguna ni legal ni ilegal en algunos casos

comparto su opinión señora llanos identificadas o no son expresiones y son

comportamientos que atentan contra los principios y valores democráticos y que el conjunto de los demócratas debemos esforzarnos en erradicar ante la violencia sea con la acepción genérica de violencia callejera

que conlleva la adopción de kale borroka o con cualquier otra expresión de violencia tenemos que insistir en varias cuestiones

contra los principios y los valores democráticos contra la convivencia pacífica contra los principios éticos y no queda otra que

repulsa ante este tipo de hechos repulsa que yo tengo

todos los representantes políticos

un avance la ertzaintza como le he dicho está

para perseguir y evitar cualquier expresión de violencia violencia que será siempre inaceptable

desde la eficiencia y la eficacia policial debemos perseguir

juzgados y condenados nunca se ha actuado de otra manera señora llanos y no lo vamos a hacer ahora ni lo vamos a hacer en el futuro generar dudas

de sus recursos de vigilancia de su reacción o de su eficacia ante la persecución del delito y de este tipo de delitos no contribuye a nada si no es

como le decía las actuaciones del departamento y de la propia siguen estando y seguirán estando como no puede ser de otra manera al servicio del sentir mayoritario de la sociedad vasca

que debemos recorrer todos juntos este es el camino

camino que desde luego no es incompatible con perseguir el delito con perseguir las acciones violentas estaremos allí donde se atente contra cualquier indicio de convivencia pacífica por tanto creo que sobra cuestionar la labor de la ertzaintza hablar de tolerancia hablar de complicidades

de una policía que ha sufrido en carne propia estos hechos porque como le he dicho en un principio creo que es tanto como
acusar de prevaricar a los propios ertzainas eskerrik asko eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta sin ánimo de teatralizar y sobreactuar he de decirle que nadie

más que este grupo para olvidar el pasado y para querer pasar página a ese pasado nadie más que este grupo y yo

en ningún momento en ninguno ahora si me está preguntando

que es usted sí desde luego que sí yo no cuestiono ni el trabajo profesional absolutamente profesional

y reconozco este grupo reconoce que han sufrido

en carne propia el terrorismo y no me diga que siempre se ha actuado así o tengo que recordarle que en alguna ocasión a los causantes de actos de kale borroka

llegó a llamarles esos chicos de la gasolina eso no es banalizar y trivializar señora consejera no me ha contestado nada

nada de qué van a hacer ustedes para impedir esos homenajes nada

no van a hacer nada porque ustedes consideran que no es delito porque ustedes consideran que perseguir esos actos sería para dar gusto a determinados grupos políticos pues mire no sería para dar gusto a la legalidad porque existe una ley que es la ley de reparación de las víctimas del terrorismo

es de dar gusto a ese cumplimiento de esa ley y

esta mañana que usted ha dicho algo así como que es el gobierno de españa el que tiene que poner en comunicación de la ertzaintza que se van a realizar determinados homenajes o que se van a producir determinadas excarcelaciones

esa policía de cercanía esa policía de proximidad pues ya le digo

a un niño de dos años había más de cien personas y estuvieron más de tres horas

usted cree que no hubo tiempo para que la ertzaintza actuase tampoco me ha contestado

qué medios piensa usted destinar para la kale borroka porque ustedes desmantelaron la unidad antiterrorista con mucha velocidad a mucha velocidad ahora eso sí para detener a una sola persona ustedes utilizaron doscientos ochenta y dos ertzainas treinta y cuatro furgonetas

eso para detener a una persona a una persona

con los hoy ausentes con la portavoz de la hoy ausente a la que ustedes también le piden y le han pedido

de la kale borroka pues bien cuántos agentes va a destinar a perseguir los actos de kale borroka y a impedir los homenajes a los etarras cuántos señora consejera quién lo va hacer en la ertzaintza la unidad antiterrorista ha desaparecido

porque yo estoy segura que hay profesionales absolutamente capacitados para hacerlo para perseguirlos

solo hace falta que haya voluntad política de querer hacerlo las dos cosas la de impedir la kale borroka

los homenajes porque tal vez usted lo que pasa es que no tiene voluntad porque no los considera homenajes lo han dicho hoy aquí son recibimientos calurosos pues mire permítame que no comparta en absoluto que recibir héroe a quien asesinó a personas y vuelve a euskadi sintiéndose absolutamente orgulloso

eso yo no sé si será delito o no para este grupo sí pero tendrán la última palabra los tienen los tribunales pero desde luego es indecente

evitar que eso se produjese señora consejera las prisas y válgame la redundancia son malas consejeras y ustedes tuvieron mucha prisa

a un mundo que todavía dista mucho de esa normalidad y de esa cultura democrática y yo no sé si ustedes lo han hecho por contentar

esas convicciones esas confluencias ideológicas pero en cualquier caso

presidente andrea bueno señora llanos voy a insistir desde la responsabilidad que me compete que la ertzaintza está no sé cómo se lo tengo que decir ya permanentemente alerta

ante cualquier vulneración de la ley para perseguir y evitar cualquier expresión de violencia violencia que como le he dicho será siempre inaceptable condenable y perseguida desde la eficacia policial ya le he dicho en mi primera intervención que en lo que va de año

ha habido en los que por presuntas que pueden clasificarse por sus indicios como presuntas expresiones de kale borroka que la audiencia nacional actuará que se ha trasladado a la audiencia nacional los correspondientes expedientes

ha trasladado esos informes a la audiencia nacional porque

porque se ha encontrado o analizado indicios que apuntan a que pueden aparecer casos de kale borroka

siempre y se seguirá actuando ha traído usted aquí a colación que hemos tenido mucha prisa en dar una imagen de normalidad

y sabemos a qué nos enfrentamos pero no tenemos miedo a abordar el futuro no nos da ningún miedo tiempos pasados para nosotros no fueron mejores desde mi punto de vista ni para nadie fueron mejores verdad pues miremos al futuro con valentía con valentía ha hablado de que hemos hecho desaparecer la división antiterrorista la división antiterrorista le recuerdo que tenía apenas tres años

y en cualquier caso aunque haya desaparecido la división antiterrorista no han desaparecido ni los agentes que ejercían las funciones ni las mismas funciones insisto

el conjunto de los ertzainas están para garantizar la seguridad

el conjunto luego me pregunta usted cuántos va a destinar

usted ha traído aquí a colación el tema de los recibimientos de los homenajes de los no homenajes y ha pretendido también trasladarme bueno que de alguna manera estaba restando importancia no le insisto

esta consejera no elabora los informes no redacta los informes ni los atestados los elabora la parte policial y usted cree

hacen su trabajo como tienen que hacerlo usted cree habla usted de prestigiar de que son ustedes los que más han prestigiado y que los que más

pues esta no es la fórmula poniendo en cuestión como se ha puesto

por destacados miembros de su partido creo que poco contribuimos así a prestigiar a la ertzaintza

autogobierno nuestra institución y la organización policial desde luego no lo vamos a permitir mire le voy a trasladar un recordatorio el pasado veinte de mayo desde su partido se generaron dudas por unos acontecimientos que habían ocurrido en legazpi el veinte de mayo dudas sobre el carácter de unos hecho violentos y también dudas sobre la respuesta de la

que actuó con cautela y con prudencia la labor investigadora que ha realizado la ertzaintza de aquel caso en concreto una labor detallada

durante varios meses ha terminado por resolver que aquello no era kale borroka como algunos pretendían evidenciar por tanto insisto tiempos pasados no fueron mejores miremos al futuro con valentía

hacía la convivencia y la paz y desde luego en ningún momento

la policía de euskadi la policía de nuestro pueblo eskerrik asko eskerrik asko

hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación otra vez de la existencia de un informe que sería desfavorable

once de octubre en relación al centro de investigación sanitaria biocruces

al parecer concluye que el centro está lejos de poderse acreditar al haberse detectado alrededor de cuarenta incumplimientos severos en el rediseño del instituto impulsado por los actuales responsables del centro tras el relevo en la dirección del mismo a mediados del mes de abril según la pre auditoria y al parecer

el modelo de instituto presentado por los actuales responsables de biocruces no cumpliría a día de hoy los preceptos mínimos para acreditarse la evaluación la propuesta presentada por distintas razones incluidas en dicho informe usted se mostró confiado el pasado día uno de octubre en sede parlamentaria en que el reformulado instituto biocruces obtendría la acreditación en los próximos meses incluso señaló la posibilidad de que lograse acreditación durante el año dos mil trece lo cierto es que esta posibilidad conocido el informe

podría ahora desvanecerse yo quería preguntarle en primer lugar si usted mantiene que la acreditación se va a poder alcanzar durante los próximos quince días es decir durante el año dos mil trece que podrá lograrse esa acreditación le señalo algunas de las cuestiones que al parecer señala este informe según

la propuesta no dota al centro de personalidad jurídica propia ni consta que vaya a disponer de financiación básica el modelo de biocruces ideado no es autónomo para gestionar sus ensayos clínicos o proyectos de investigación

económica y organizativa algunos de los aspectos más cuestionados ya digo su gestión económica y su situación jurídica se habla de falta de autonomía y excesiva dependencia de bioef

a la ausencia de datos sobre el presupuesto para el año dos mil catorce o el cierre económico previsto para dos mil trece

biocruces carecería de la personalidad jurídica propia que le dote le pueda dotar de una autonomía suficiente

a una acreditación de excelencia tampoco queda bien definida la función y aportación de las distintas instituciones que conforman biocruces

biocruces carece de director científico biocruces no ha remitido el plan estratégico al comité científico externo para que lo evalúe

no le han remitido las memorias científicas económicas y de gestión en fin

la acreditación es condición necesaria para obtener financiación y poder desarrollar proyectos de investigación que situarían a nuestra comunidad autónoma a la vanguardia de la investigación biosanitaria queremos preguntarle sobre las medidas que tiene previsto tomar

la acreditación del instituto carlos tercero cuándo cree usted que podría

a la vista del informe que ha aparecido parte de él en algún medio de comunicación nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on quisiera iniciar la intervención fijando algunas ideas muchas ya expresadas en la comparecencia creo que amplia y extensa

del departamento de salud en la correspondiente comisión de salud y consumo hace apenas dos meses para informar de la reflexión llevada a cabo sobre biocruces

no he cambiado mis ideas legegintzaldi honen hasieratik

nosotros hemos defendido permanentemente que lo importante en la investigación es su modelo

y lo hemos defendido como usted creo que conoce desde el primer día estamos convencidos de que en el punto que estaba biocruces al inicio de esta legislatura

debía dirigirse a la acreditación para ello hemos trabajado este año y lo seguimos pensando y trabajando hemos defendido permanentemente

no se puede desligar del propio hospital y no debe ser investigación básica sino investigación traslacional y en esta línea seguimos trabajando

o menos escucharlo me resulta difícil de entender su cambio de postura su cambio de postura

creo que es la primera vez que me lo pregunta sino la construcción del edificio ahora centra su interés en el contenido del informe que veo que conoce mucho más profusamente que lo publicado en el periódico porque yo he leído los artículos de prensa y no he sacado tanta información como la que usted me muestra

el informe no es más que un paso importante hacia la acreditación de biocruces como instituto permítame

en la comisión de salud y consumo hace unos pocos

y dijo textualmente y en todo caso le termino deseando

y que el proyecto de construcción del edificio se inicie y termine también cuanto antes porque tal y como nosotros venimos defendiendo y aquí me dijo usted lo importante

celebro que hoy estemos ya en el modelo de investigación su interpelación

que ha leído el artículo del periódico mucho más profusamente

el informe en el apartado titulado medición análisis mejora protección y difusión de

dentro del plan estratégico dos mil trece dos mil diecisiete

se encuentra en fase de reubicación de sus equipos científicos y recursos físicos

aunque en estos momentos ya cumple con los requisitos de espacio y equipamiento se lo voy a repetir aunque en estos momentos

es apoyar la investigación y la salud en euskadi le pediría un debate sosegado y con espíritu constructivo

de acreditar el instituto le garantizo que ni este gobierno ni este departamento van a hacer de la investigación

al proceso de acreditación de un instituto de investigación sanitario y a sus sucesivas renovaciones y auditorias

es su carácter dinámico objeto de revisión participación y mejora continua a cargo de todos los agentes implicados la valoración puntual

puede tener algo de valor pero es fácil que nos de una visión totalmente distorsionada cuando no errónea de la realidad de un proceso cuya principal característica como ya le he dicho

de institutos de investigación sanitaria está regulada por el real decreto trescientos treinta y nueve barra dos mil cuatro y sometida a la interpretación del instituto carlos tercero

y también las fases del procedimiento pues bien en estos momentos dentro de este procedimiento nos encontramos en la fase denominada de autoevaluación

realizó la visita previa conviene aclarar que pre auditoria no es un nombre correcto a pesar de que se utilice habitual

como así se denomina el informe el informe de visita previa se hace en una fase del proceso de acreditación de los institutos como puede observarse

la visita previa es por tanto un paso del proceso que lleva a la acreditación

asesorar sobre los pasos seguidos para la acreditación con las mayores garantías de éxito valorando la pertinencia y el momento adecuado para solicitar la auditoria el informe de visita previa ni acepta ni rechaza propuestas oso garrantzitsua da gauza bat argi izatea hasierako bisitaren txostenak

biocruces al igual que cualquier otro instituto antes de ser acreditado precisa adecuar su estructura y funciones al real decreto citado

estructurar procesos y estandarizar procedimientos para en su día solicitar la acreditación lo importante del informe de la visita previa es que guía y orienta sobre los pasos a seguir y permite

identifica áreas en las que se sugiere que biocruces debe intensificar determinadas acciones y esto se dice así precisamente porque se trata

e incorrecciones que contiene la justificación de su interpelación en resumen el instituto de salud carlos tercero no ha llevado a cabo una pre auditoria sino una visita previa tal como se contempla

para llegar a la acreditación el informe no es favorable ni desfavorable es sencillamente un informe de situación el informe de la visita

ni tampoco concluye que se hayan detectado cuarenta incumplimientos severos concluye que hay aspectos que precisan mejorarse usted señor maneiro que tanto interés muestra por este asunto sabrá que la visita previa es indispensable en el proceso de acreditación seguro que también conoce que biocruces nació en el año dos mil cinco y nació con la idea de ser un instituto de investigación

pues hasta este año no se había firmado el acuerdo del instituto con la upv

saque usted mismo las conclusiones sobre nuestras intenciones no ha habido evaluación y lo que usted llama evaluación no es sino la visita previa a la acreditación por lo tanto señorías la posibilidad de la acreditación no se desvanece

es más en nuestras conversaciones con el instituto carlos tercero que hemos tenido varias

que suponga un problema no subsanable para la acreditación para terminar permítame recordarle que hace unos meses

de la comisión de salud y consumo pero en aquella ocasión pese a la consideración que según sus palabras le merece este proyecto para el futuro de euskadi

en doce comisiones intervengo en todos los puntos de todos los ordenes del día de los plenos ordinarios e intervengo cuatro o cinco veces en los plenos de control trabajo no sé cuántas horas al día preparo interpelaciones en fin soy el azote del gobierno señor consejero y además

para visitar biocruces que efectivamente hubiera sido muy interesante me hubiera gustado acudir pero no llego a todo no llego a todo señor consejero pero lo intentaré

a esto incluso por las noches señor consejero yo tampoco soy el gobierno y usted al principio sobre todo de su intervención parecía que usted estaba haciendo una labor de control

rescatando frases de un servidor aquí o allá en diferentes comisiones y analizando qué era lo que proponía upyd en relación a este asunto lo importante es qué es lo que propone el gobierno y cuáles son las medidas que va a proponer a partir de ahora tener en cuenta lo que dice este informe que efectivamente no es definitivo para tomar las medidas correctoras y que biocruces pueda ser acreditado cuanto antes esto es lo que nosotros queremos no queremos otra cosa yo tampoco le he señalado que biocruces no haya logrado la acreditación digo que hay un informe que efectivamente señala algunos asuntos que hay que mejorar es simplemente esto yo creo que hay margen de mejora y además

tampoco sabemos exactamente qué es lo que dice el informe porque usted lo tiene escondido bajo siete llaves y eso también sería una buena pregunta dónde está el informe y si este informe hubiera sido favorable

nuestra sospecha es que usted hubiera dicho que vamos por el buen camino y que ese informe es muy favorable pues el informe que tenemos no parece que sea favorable

la pregunta es por qué lo tiene guardado bajo siete llaves por qué no nos lo ha entregado a los grupos parlamentarios por qué no se lo ha entregado a los investigadores

estas preguntas por qué no sabemos nada de él por qué no se lo entrega a los grupos para que podamos analizarlo a fondo y conocer exactamente qué es lo que dice este informe en lugar de y poder informarnos a través de los medios de comunicación y por qué le quita si es un informe que trata de ser como decía usted una guía de mejora pues bueno vayamos a conocerla efectivamente y que entre todos podamos ser capaces de impulsar todas esas mejoras que son indispensables en todo caso qué pasos va a dar qué medidas va a tomar qué nuevos plazos manejan para la acreditación

dos mil trece o principios de dos mil catorce y por cierto por qué pidió al instituto carlos tercero que le escribiera una carta más amable en relación al informe y también si va a leernos esa carta ahora también le pregunto si va a leernos esa carta en todo caso

y no solamente nos leyera sino que nos entregara el informe en lugar de tenerlo

mire este parlamento con el voto del partido nacionalista vasco y eh bildu aprobó un transaccional que decía lo siguiente proponía instar al gobierno vasco a que se comprometa a seguir impulsando

al objeto de poder cumplir todos los requisitos exigidos por el instituto de salud carlos tercero para obtener la acreditación como instituto de investigación sanitaria durante este año se aprobó aquí en el parlamento con la firma del partido nacionalista vasco va a cumplir usted

mire lo que decía el portavoz del grupo nacionalistas vascos instamos al consejero

el instituto pueda acreditarse como centro de investigación sanitaria es lo que nosotros le pedimos va a cumplir esta iniciativa esta proposición no de ley que se aprobó en este parlamento va a ser posible que este instituto sea acreditado cuándo va a ser acreditado qué medidas correctoras va a impulsar esto es lo que a nosotros nos interesa nosotros queremos que este instituto pueda ser acreditado

lo queremos pero la labor de la oposición es preguntar al gobierno cómo van las cosas para instarle

queremos que biocruces reciba la acreditación es más posiblemente la reciba finalmente seguramente sí pero bueno hay un informe que no es favorable

y no se van a cumplir los plazos a los que usted se comprometió no se van a cumplir nada más gracias un placer

la verdad es que sin animo de polemizar tengo que reconocer que

el instituto se va a acreditar y lo vamos a ver usted y yo y luego sírvame la tribuna también para estar usted invitado en el momento que sus múltiples ocupaciones se lo permitan

al instituto biocruces para que pueda hablar con los investigadores que usted quiera

por los medios de comunicación otra vez creo que debería usted no decirme lo de otra vez porque yo no he hablado de biocruces en los medios de comunicación durante este año y es más comparecí en la comisión en octubre a petición propia

oculto el informe mire no ocultamos nada el informe creo que me lo han pedido en el parlamento y vendrá la semana que viene pero en cualquier caso

de cada informe que alguien nos puede hacer para acreditar una iso un tema de calidad

de treinta y cuatro horas por lo tanto no sé por qué tiene que venir ese informe que no es más que un informe de previsita

que nosotros en ese aspecto mantenemos absoluta transparencia bien me decía qué vamos a hacer bien

que estoy seguro coincido con todos ustedes en que es el proceso de acreditación y que esta sigue su curso

biocruces está actualmente estudiando la fórmula jurídica más

y el informe no dice que no cumpla la fórmula jurídica

la legislación que tiene una época y por otro lado está el criterio actual que parece

para ello precisa tener elaborado los estatutos sociales y un régimen de reglamento interno

en él asociadas en particular con la universidad del país vasco y en ello se está trabajando también se está trabajando en aspectos como el presupuesto nos han pedido

no tenga presupuesto nos han pedido un presupuesto diferenciado del hospital de cruces como no tiene entidad jurídica propia a día de hoy su presupuesto está en el del hospital no supondrá un problema nos han pedido que complementemos

de los últimos cinco años o sea desde el dos mil cinco al dos mil doce como usted sabe

el diecisiete de diciembre de dos mil doce estamos completando la documentación y especialmente estamos estudiando si finalmente es indispensable el cambio de vinculo jurídico una vez completados estos trabajos pasaremos a la fase de validación

formalmente la auditoria y sí es probable que no lleguemos a solicitar la auditoria en estos quince días del año es probable entiendo que el problema no será en un instituto creado desde el dos mil cinco si se solicita la auditoria antes del treinta y uno de diciembre o antes del veintiocho de febrero

y también nuestro compromiso con la investigación en ciencias de la salud y con los investigadores

en que la acreditación se conseguirá quiero finalizar leyéndole textualmente

lo que dicen sobre la investigación que se realiza en biocruces y le leo textual

se ha constatado la calidad de la investigación realizada en el hospital y sus vínculos con los grupos de investigación básica de la upv lo cual nos parece sin género de dudas

zaballos jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señora consejera
en dos mil doce el ministerio de fomento recortó el presupuesto destinado a las obras de la y vasca en un cuarenta por ciento

dejando la asignación en ciento noventa millónes para las obras de su competencia pero por si fuera poco el recorte realizado por el ministerio en dicho año a finales del dos mil trece nos encontramos con que el gasto ejecutado de las obras habrá sido de noventa millónes es decir el cuarenta y siete por ciento de lo previsto los hechos demuestran la evidente falta de apuesta por parte del gobierno central en la y vasca y teniendo en cuenta que el ramal guipuzcoano es competencia del gobierno vasco vía encomienda de gestión

de los diecisiete tramos en la actualidad está abordando el gobierno vasco entre bergara y astigarraga

un tramo a recepcionar en dos mil trece ezkio beasain se ha solicitado la recepción en noviembre del dos mil trece cuatro tramos previstos para concluir en el primer semestre del dos mil catorce

cuatro tramos previstos concluir en el segundo semestre del dos mil catorce

y seis tramos restantes que tiene previsto concluir que tenemos previsto concluir a finales del dos mil quince o como mucho a principios del dos mil dieciséis

estos objetivos responden a la planificación de obras que se ha ido realizando desde que se firmó

dos mil seis al que nosotros estamos dando respuesta con lealtad y con eficacia eskerrik asko oregi andrea

muchas gracias señora consejera a los socialistas nos preocupa la actitud del ministerio de fomento

y por eso traeremos la semana que viene a pleno el debate de una proposición no de ley mediante la cual instaremos al gobierno de españa a que la encomienda de gestión firmada en dos mil seis

con el objetivo de que todas las obras de plataforma de toda la red en el país vasco estén concluidos antes de finales del dos mil seis pero de nada sirve que el gobierno vasco asuma

si lo va a ejecutar de la misma forma que está ejecutando los tramos guipuzcoanos

de nada sirve que contemplen trescientos cincuenta millónes en los presupuestos destinados a la y

dos mil doce con las partidas y créditos de gestión que ustedes han establecido en el proyecto de presupuestos para el dos mil catorce nos encontramos por ejemplo en el presupuesto dos mil doce las obras de tramo tolosa hernialde finalizaban en el dos mil trece

es decir el tramo de obra lleva un año de retraso por un valor de trece millónes de euros que no se han ejecutado en tiempo

y para ustedes en dos mil dieciséis dos años de retraso y más de cien millónes no ejecutados en tiempo

para ustedes dos mil dieciséis un año de retraso sesenta y ocho millónes no ejecutados en tiempo

para ustedes dos mil catorce un año de retraso diez millónes no ejecutados

para ustedes en dos mil quince es decir un año de retraso en cada tramo veintisiete millónes en uno

en otro y suma y sigue señora consejera sabemos que las comparaciones son odiosas pero el gobierno vasco del lehendakari ibarretxe

hasta que hubo el cambio de gobierno es decir en tres años solo licitó un tramo en cambio el gobierno vasco del lehendakari lópez en tres años y medio licitaron la totalidad de los tramos aquí está la muestra de lo que es apostar realmente por el tren de alta velocidad

de los tramos por favor no cometan los mismos errores que cometieron sus compañeros de partido cuando gobernaban o que está cometiendo el ministerio de fomento

no cese su trabajo hasta lograr que la ejecución de los tramos guipuzcoanos se realicen en tiempo que los tramos vizcaínos y alaveses sean incluidos en la encomienda de gestión de dos mil seis

sea una realidad cuanto antes y no algo olvidado por parte del ministerio de fomento muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna erantzuteko oregi andreak dauka hitza

sí señor zaballos no sé muy bien cuál es su pregunta no sé si su pregunta es qué pasa con las obras en los tramos que está gestionando adif

el gobierno vasco en cualquiera de los casos le diré que el gobierno vasco está cumpliendo como he dicho antes con lealtad y con eficacia con el convenio suscrito en el año dos mil seis y también sabe usted que la primera parte una vez que se firma un convenio y se pone en marcha una obra de esta envergadura y

la primera parte del tiempo se emplea en hacer proyectos en preparar suelos en conseguir autorizaciones etcétera durante los primeros tiempos de vida de este convenio se realizaron todas esas cuestiones a partir de ahí y siguiendo un tránsito

llega el momento de las adjudicaciones llega el momento de la puesta en marcha de las licitaciones y adjudicaciones y posteriormente llega el momento de las ejecuciones cuando las licitaciones y las adjudicaciones se han hecho bien se han tenido en cuenta todas las autorizaciones pertinentes se han tenido en cuenta

las obras discurren con tranquilidad con calma y dentro de los esquemas previstos cuando se ha intentado correr demasiado a veces ocurre que hay que hacer

o también con reformados o con modificados eso es la vida normal de un convenio y de las obras de estas dimensiones en eso estamos y nuestro compromiso es que en el año dos mil dieciséis la plataforma y la obra civil de toda la obra encomendada al gobierno vasco va a estar terminada evidentemente

que se van solucionando con normalidad y con tranquilidad y que estarán terminados en el año dos mil dieciséis como vengo reiterando una y otra vez otra cuestión son

zonas que está trabajando el ministerio de fomento a través de adif y ante esto me alegra saber que usted también quiere poner su granito de arena para que el ministerio y adif trabajen lo más ágilmente posible liciten las obras que faltan del nudo de bergara que es lo que realmente nos preocupa y no nos despistemos con otras cuestiones y nos enredemos